propuestas de resolución de los demás partidos y sin ánimo de querer minusvalorar las demás propuestas que algunas de las mismas entendemos

a votar creo que el partido popular en este pleno

un claro ejercicio de ambición y de realismo planteando propuestas absolutamente realistas y que inciden en los problemas

me voy a detener en algunas de las propuestas pero sobre todo quiero

en una propuesta que además va en la línea de la convergencia con la unión europea tanto que le gusta mirar al señor lehendakari y a su gobierno a europa yo creo que

es una buena referencia mirar lo que está pasando en europa y además creo que es una cuestión de clara voluntad política

y cuando hay dinero se trata de priorizar y creo que las políticas de

y un gobierno que se erige como el gobierno de las personas tendría que hacer muchísimos más esfuerzos

y en política también de ayudas a las familias si queremos converger con europa

quedarnos atrás y quedarnos atrás además de los propios planteamientos que ha hecho este gobierno ya en la pasada legislatura nosotros proponemos un cheque fiscal vinculado a la declaración de la renta independientemente de su resultado por importe de mil doscientos euros por cada hijo menor de dieciocho años que conviva con el contribuyente

de la renta independientemente de su resultado sin duda

hace hincapié realmente en abordar el tema de las ayudas a las familias en línea con la convergencia con europa

a europa plantearíamos que ese

euros se sumaría a la deducción actualmente existente por hijo

euros más las deducciones que actualmente existen por hijo estamos hablando

más quinientos noventa y cuatro euros de deducción por el primer hijo por el segundo serían setecientos treinta y cinco más los mil doscientos y por tercero mil doscientos cuarenta y dos más los mil doscientos por mil cuatrocientos sesenta y siete más mil doscientos por el cuarto

por importe de mil doscientos euros por cada hijo menor de dieciocho años que se añadiría a las deducciones actualmente

el cheque fiscal creemos además señor lehendakari y aprovechando que usted está presente ahora en este debate

política y si usted se erige

esto es una mera cuestión de voluntad política y le voy a decir por qué la recaudación en febrero de dos mil diecisiete fue del siete por ciento la previsión del consejo vasco de finanzas fue un cuatro por ciento estamos hablando de lo que plantea el partido popular este cheque fiscal de mil doscientos euros por cada hijo menor que se añadiría como digo a las cuantías que antes he señalado

actualmente existente por el número de descendientes supondría unos cuatrocientos cincuenta millónes de euros que está

en la recaudación y por lo tanto creo señor lehendakari que esto es una cuestión de mera voluntad política estamos hablando de un tres coma cinco por ciento de la recaudación cuando ustedes es decir esos cuatrocientos cincuenta millónes de euros representarían un tres coma cinco por ciento de la recaudación cuando ustedes respecto a las previsiones que eran de cuatro por ciento

han tenido una recaudación del siete por ciento por eso le digo señor lehendakari que si usted cree en las familias

en sus problemas si usted cree en la convergencia con europa tanto que le gusta mirar a europa

lo que se está haciendo en los países de la unión europea y no tiene más que mirar las posibilidades que tenemos de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico y de acuerdo a

de recaudación que como le digo han sido superiores a las previsiones en el consejo vasco de finanzas que han sido de un cuatro por ciento

ayuda y esto es la verdadera convergencia con europa es absolutamente factible en relación

que tiene este gobierno y las previsiones de recaudación previstas es una cuestión de mera voluntad política

hijo menor de dieciocho años como cheque fiscal vinculado a la declaración de la renta

a las deducciones actualmente por descendientes por lo tanto creo que es un objetivo realista creo que es un objetivo que como sociedad

y al que podemos ambicionar señor consejero señor lehendakari es cuestión de prioridades y desde luego la prioridad del partido popular una de ellas

significativa en línea con lo que se está haciendo en europa es esta cheque fiscal vinculado a la declaración de la renta independientemente de su resultado por importe de mil doscientos por cada hijo menor de dieciocho años

a las cuantías a las deducciones actualmente existentes por cada descendiente tengo que decir en este sentido que hay una propuesta

parecida no sé si parecida o similar por parte de eh bildu porque no la he acabado de entender bien pero que se queda bastante corta porque habla de mil quinientos euros anuales y con la propuesta del partido popular

que si se añaden a las deducciones actualmente por descendiente superamos ampliamente la cuantía que establece el grupo de eh bildu

euros por lo tanto creo que es mucho más realista nuestra propuesta creo que además

posibilidades de recaudación que hemos tenido que han sido superiores a las previstas a las propias previsiones del consejo vasco de finanzas señor lehendakari señora consejera es una cuestión de mera voluntad si ustedes sitúan a las familias vascas como prioridad de las políticas de este gobierno desde luego no podían desechar como han desechado esta propuesta del partido popular ustedes saben que en materia de ayudas a las familias muy cortos ya no es porque no hayamos convergido con europa que estaba previsto en el plan que ya ha acabado su vigencia sino que nos hemos quedado muy atrás de las propias previsiones que contemplaba

son muy rácanos y son nada ambiciosos para la situación

vasco tenemos como tenemos la tasa de natalidad tenemos como tenemos el índice

han planteado muy poca ambición y han sido señor lehendakari absolutamente conformistas y eso se lo digo al gobierno que se ha erigido en todo momento en el gobierno de las personas desde luego las familias con sus problemas con sus necesidades creo que no ha estado en la primera línea de acción política de este gobierno le digo señor lehendakari

de la que ustedes han previsto y de las contempladas en el propio consejo vasco de finanzas publicas estamos hablando de cuatrocientos cincuenta millónes de euros estamos hablando además de un reparto entre las distintas instituciones

de converger con europa y si nos queremos mirar al espejo de europa

claramente nos vamos a quedar atrás mejor dicho señor lehendakari nos hemos quedado atrás

eso es nuestra principal propuesta sí que lamento que finalmente no ha sido posible un acuerdo con algunos otros grupos con podemos eh bildu sí les llamo también a la reflexión

que pondríamos encima de la mesa que además en línea con los países más avanzados de europa podría solucionar los problemas

de nuestra población señor lehendakari es una cuestión de voluntad política por lo tanto no me diga que el gobierno de las personas no podía hacer un mayor esfuerzo en las familias vascas que se conforma

cuando las cifras están ahí y cuando usted sabe que cómo tenemos los índices y desde luego en algunas materias estamos

en relación a los países más avanzados de la unión europea y que han detectado estos problemas ya hace tiempo esta es nuestra principal propuesta yo sigo llamando a la reflexión a la posibilidad de que haya una aproximación entre el grupo eh bildu y podemos en relación a esta propuesta porque no sé si en este momento pero podamos avanzar en esta línea porque ya digo además es la línea

los países de la unión europea con sistemas de ayudas hasta los dieciocho años universales algunos países mucho más allá hasta los veintiuno años y desde luego

este gobierno el converger con europa en el tema de las ayudas a las familias y a las familias con hijos y da la sensación que por las propuestas

de legislatura del partido nacionalista vasco porque en los que luego hemos visto plasmado

hay muy poca ambición en el tema de las políticas hay demasiado conformismo y poca ambición señor lehendakari para un gobierno que se erige en el gobierno

que usted quiere representar a las familias vascas porque no se corresponde con la realidad y con la realidad que va a salir hoy de este pleno por falta de ambición de realismo del partido nacionalista vasco y del partido socialista que son los partidos que forman parte

esta desde luego es nuestra propuesta más significativa a la mañana me he detenido en otras me voy a detener ahora en otras pero creo que es un objetivo que se puede conseguir teniendo en cuenta los excedente de recaudación teniendo en cuenta las propias previsiones del consejo vasco de finanza y creemos señor lehendakari ya que está hoy sentado aquí es un cuestión de mera voluntad política

en el centro de su actividad política usted hablaba en precampaña electoral de doscientos millónes de euros

no tenemos el plan no tenemos los doscientos millónes no sé desde luego dónde queda su palabra señor lehendakari pero en materia

que queda bastante en duda y desde luego lo siento por las familias vascas porque este gobierno demuestra una clara falta de ambición y desde luego aquí el espejo señor lehendakari

serán otros pero desde luego no son su espejo a la hora de poner en marcha políticas de familia esta es nuestra propuesta de las más significativas pero también paso a detallar algunas otras que he señalado esta mañana nosotros

en el que aparece en una esquina la señora consejera pero creemos que es posible un pacto mucho más ambicioso por la conciliación y por la igualdad y que pongan en el centro de acción política el reto demográfico y las políticas de infancia y de familia

interinstitucional de apoyo a las familias es un plan

y no quedarse en lo grueso y desde luego establecer sistemas de evaluaciones y desde luego las consignaciones económicas

que las previsiones en relación a las ayudas a las familias han quedado claramente incumplidas pensamos también

todo el día señor lehendakari hablando de las personas y del centro de actuación tienen que ser las personas y luego cuando el partido popular plantea una propuesta

con una sociedad moderna con una sociedad que tiene ambición y con unos objetivos en relación a las políticas

pues debería introducir la cuestión del impacto de género en la normativa que se elabore por parte del gobierno vasco

importante que se contemple y se elabore por parte de este gobierno una guía para

que se disponen para las familias vascas creemos también que hay que dotar de contenido al observatorio de la familia es un observatorio

se detiene y echamos un vistazo desde luego creemos que hay que

refleje claramente la radiografía de la realidad la situación y problemática de las familias vascas hablaba del cheque fiscal vinculado a la declaración de la renta independientemente de su resultado

que se sumarían como decía anteriormente a las deducciones actualmente previstas por primer hijo ya quinientos noventa y cuatro segundo setecientos treinta y cinco tercero mil doscientos cuarenta y dos y cuarto mil cuatrocientos sesenta y siete es decir sería esas cantidades

euros creo que el escenario económico nos lo permite y creo

de las familias vascas nos la demanda señor lehendakari proponemos también incrementar las ayudas por la conciliación incrementar también las deducciones por ascendientes también entendemos que es necesario llegar a una mayor armonización de las normas

y sí tengo que decir que hay alguna otra propuesta del grupo eh bildu en relación a la gratuidad en la educación pero que nos parece que también se queda bastante corta porque nosotros hablamos de la gratuidad del primer ciclo de educación infantil concertado en el tramo de dos a tres años y avanzar progresivamente en la eliminación progresiva de las cuotas en el tramo de cero a dos años

de dicha etapa para el conjunto del sistema educativo creo que es otra de nuestras propuestas estrellas ambiciosas y desde luego que son factible de acometer si estamos preocupados

por el problema de la natalidad por el problema de la conciliación señor lehendakari creo que no son medidas para despacharlas

argumento planteamos también crear un distintivo a euskadi concilia para autónomos pymes y grandes empresas que implementen medidas que favorezcan la conciliación de la vida laboral y personal de sus trabajadores

que se puedan impulsar desde las instituciones creemos también y es una demanda que nos ha llegado desde distintos colectivos y hemos visto que también

para configurarlo realmente como una herramienta efectiva de apoyo y acompañamiento en materia de conciliación a las empresas también

con necesidades educativas especiales también campañas de información medidas de promoción de teletrabajo

medidas para prevenir las diferentes violencias también actuaciones para la prevención de adicciones y drogodependencias también para el cuidado de las personas mayores en su propio domicilio también situaciones de medidas y mecanismos para la prevención abordaje y seguimiento

y adolescencia en definitiva señor lehendakari señora consejera pero me voy a referir sobre todo al señor lehendakari porque su gobierno

usted con las propuestas del partido popular a las que algunas de ellas me he detenido de forma bastante exhaustiva tiene una oportunidad de hacer

a cabo en los años que lleva como lehendakari y tengo que decirle lamentablemente y no para el partido popular sino para la sociedad vasca y para las familias vascas

en materia de convergencia con europa que era uno de sus objetivos tienen un clamoroso suspenso miren más las enmiendas del partido popular que intentan subsanar
dirección absolutamente equivocada y no en la línea de los retos que tenemos como una sociedad moderna y avanzada nada más muchas gracias eskerrik asko garrido andrea

también habíamos planteado algunas medidas en relación a las políticas de vivienda y al que se pudiera ejercitar el derecho subjetivo a la vivienda sobre todo centrándonos en que por lo menos no se dé como prioritaria la sustitución

del derecho a una vivienda por la prestación

ese derecho no porque de alguna forma eso implica vaciar de contenidos un derecho que es subjetivo y además que consideramos que la cuantía también debería ser revisable esa cuantía de esa prestación que sustituye al derecho

no es una cuestión de quién tiene más o menos porque la verdad es que las evaluaciones del plan tampoco son para echar cohetes con lo cual pues si el cuarto es el primero en una nueva dirección la verdad es que sí será para echar cohetes

y ahí veremos si realmente todo eso que se plantea en el pacto pues es verdad

para apoyarlo y para seguir adelante y veremos

como ya avanzábamos en nuestra primera intervención

el debate en torno a las políticas demográficas y el relevo generacional las condiciones para una vida digna

el bienestar de la infancia y de las personas adultas mayores y para ello

las problemáticas que se deben abordar son muchas para eso presentamos una batería de propuestas que apuntan a intervenir sobre distintos ámbitos de las políticas públicas y por consiguiente

seguimos hablando consideramos en primer lugar que para hablar de familia es imprescindible como ya hemos dicho

proponemos por lo tanto generar espacios de diálogo y de participación espacios de debate en torno a esas políticas necesarias de carácter social y demográfico

a la futura modificación de la ley de atención a la infancia en torno al derecho de las personas con diversidad funcional

proponemos también que en este debate la vida digna y el bienestar estén presente

hoy de niñas niños adolescentes personas adultas y adultas mayores en el centro de las políticas y en su bienestar como un fin en sí mismo no como una estrategia para resolver el relevo generacional

en este sentido reiteramos que se debe eliminar el injusto recorte del siete por ciento

debe incrementar el ocho por ciento aunque ya sabemos que esto no va a salir aprobado

o suspendidas al ser su único sustento o su única vivienda planteamos también que se creen servicios de respuesta para familias en situaciones de emergencia habitacional

emplazamos a las diputaciones a que implementen un modelo de fiscalidad centrado en el interés superior de las niñas niños y adolescentes con perspectivas de género y que asegure la redistribución de la riqueza proponemos que se amplíe los campos de estudio en materia de transmisión intergeneracional de la pobreza pobreza encubierta proponemos que se garantice el acceso

y también acceso específico garantizado a las personas con diversidad funcional proponemos a todas las instituciones vascas a que aseguren los derechos y servicios y prestaciones de niñas niños y adolescentes

supone la pérdida de la riqueza de capacidad de desarrollo y de vidas más vivibles para todas también creemos que las mujeres la igualdad y la corresponsabilidad son imprescindibles

ponemos los cuidados como un derecho de todas y lo más importante como una responsabilidad pública

y estado en el sostenimiento de la vida las familias pueden convertirse en un elemento de presión y sobrecarga especialmente para las mujeres

a un sector feminizado que hoy por hoy asume invisible y en una precariedad alarmante

mujeres profesionales de los cuidados no reconocidas por la normativa ni como profesionales ni como trabajadora con un régimen especial que no debería existir en nuestro tratamiento jurídico para ello proponemos medidas para que se abran espacios

los permisos parentales iguales e intransferibles y cien por ciento remunerados emplazamos a las diputaciones a designar recursos al desarrollo de la legislación vigente en materia de dependencia y a todas las administraciones en materia de servicios sociales proponemos a todas las instituciones desarrollar políticas de servicios y prestaciones específicas de apoyo

para contribuir a eliminar los fenómenos interrelacionados como son la feminización y la infantilización de la pobreza consideramos que la infancia y su protección deben ser una prioridad de las políticas

porque son presente y futuro y el mundo que construimos es para las niñas y los niños por eso

el niño y el adolescente el de la igualdad de trato y no discriminación el de la igualdad de oportunidades y el de la equidad proponemos que en el plazo de seis meses se realice un plan que fortalezca de verdad

el observatorio de la infancia y la adolescencia fundamental para que se realicen los informes periódicos que evalúen el trabajo en torno a la infancia en la administración pública vasca consideramos que también las personas mayores deben ser una prioridad de estas políticas demográficas y de familia y asistimos a una precarización de sus ingresos devaluación de las pensiones que parece no tener fin

y también que pueden necesitar de cuidados que asumen las hipotecas que asumen los alquileres o que abren sus casas cuando la precariedad azota

al igual que el defensor del pueblo ha advertido ayer mismo que

que reconoce en el derecho de los ciudadanos unas pensiones que garanticen su suficiencia económica el gobierno vasco debe tomar medidas concretas para no dejar en la estacada a las y los pensionistas que no llegan a un ingreso para una vida digna proponemos medios y herramientas para hacerlo no resolverá el problema de fondo es cierto pero no se puede dejar

solas ante decisiones políticas que ponen en riesgo su bienestar la juventud los proyectos de emancipación y

en este sentido todas hemos escuchado de ingenieras enfermeras médicos o sociólogos

porque mejor seguir formándose mejorar el idioma que estar aquí de brazos cruzados para ello políticas efectivas

para desarrollar proyectos de vida que merezcan la pena ser vividos participación de las personas en el proceso de desarrollo de la ley de juventud y mejoras en el empleo empleo que por otro lado digno y de calidad porque con la precariedad la temporalidad la imposibilidad de conciliación las condiciones laborales que exprimen la vida de muchas personas

no se puede tener seguridad y muchas veces tampoco se puede tener futuro hay que repensar el modelo productivo las relaciones laborales

porque es necesario para tener esas vidas que buscamos y segundo

para ello proponemos que en el marco de la estrategia de empleo eje vertebrador de las políticas públicas en este ámbito se incorporen medidas necesarias para garantizar que se cuantifica el trabajo reproductivo se garantice la puesta en marcha de medidas que avancen hacia la corresponsabilidad entre hombres mujeres familia comunidad mercado y estado en el reparto de la responsabilidades

la calidad de los empleos a través de cláusulas sociales y en los contratos públicos proponemos que se fomente el contrato relevo la jornada laboral de treinta y cinco horas y el estricto control de la legalidad en la jornada horas extraordinarias derechos deberes y oportunidades asociados a los cuidados

poniendo una atención especial en los sectores feminizados y precarizados como el de las trabajadoras de hogar consideramos que la salud de todas y todos y especialmente atendiendo a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres

para ello proponemos medidas para que las personas encuentren facilidades

para acceder a los medios de reproducción asistida proponemos también el fortalecimiento de políticas de educación afectivo sexual de salud sexual y reproductiva así como la revisión y mejora de la accesibilidad

sociedad y familias libres de violencia porque las violencias machistas también dificultan que creemos proyectos de vida

de igualdad proponemos que todas las instituciones asuman como objetivo central lograr una sociedad libre de violencia

protección y reparación del daño proponemos desarrollar también y fortalecer servicios de justicia centrados en las necesidades de estos niños niñas y adolescentes proponemos que hablemos de educación en mayúsculas porque invertir en educación en todos los niveles de la vida

es fundamental para poder hablar de proyectos de futuro para ello

asegure una educación gratuita pública de calidad desde los cero años medidas

proponemos también medidas para que las instituciones vascas garanticen el acceso al uso inclusivo y de calidad y también el acceso al aprendizaje del euskera pero no solo es necesario hablar en políticas de familia sino también de las idas y las vueltas de las migraciones

jóvenes o no tan jóvenes que han tenido que marcharse por necesidad o por voluntad

por las idas y las vueltas de este mundo globalizado las familias mixtas interculturales

para ello proponemos que se ajusten las políticas de retorno porque hay muchas personas que han tenido que marchar y debemos facilitar que vuelvan si es su deseo poniendo a su disposición medidas suficientes para todas no solo para las que nos resulten útiles

la condición de vecinas y vecinos que son eliminando trabas legales y burocráticas que encuentran en su día a día en el ejercicio de los derechos y prestando especial atención

que acumula factores de vulnerabilidad que dificultan sus vidas su desarrollo y sus derechos

es hablar de qué tipo de sociedad tenemos y queremos es hablar de derechos y de bienestar

acompañen a las personas protejan y garanticen vidas dignas para poder elegir presente y futuro para ello hoy ponemos sobre la mesa cincuenta y uno propuestas

cincuenta y uno propuestas orientadas a poner en común el bienestar apuntamos a resolver problemáticas clave para la sostenibilidad de la vida

y en resumen para que las familias dejen de ser ese chaleco salvavidas del que hablábamos a la mañana y sean un soporte más no el único para que todas las personas que integran hoy en el futuro

ser vividas por eso hoy vamos a ser muy críticas con nuestro voto pero también responsables y coherentes con un compromiso firme y claro con el bienestar de las familias y de la infancia

eh bildu es por ello que vamos a votar de forma favorable a todas sus propuestas votaremos también favorablemente

dado que son interesantes y necesarias pero en las demás nos vamos a abstener

pero realmente somos críticas con la forma y consideramos que son poco ambiciosas para las necesidades que tenemos por último votaremos que no a diecinueve de las resoluciones del partido popular por entender que es en la base donde se plantea las diferencias

las familias no siempre concretamente nos gustaría destacar nuestro no rotundo a la primera de las resoluciones del grupo populares vascos porque no se puede señora garrido hablar de un pacto por la conciliación y la igualdad poniendo en el centro el reto demográfico y las políticas de infancia y familia un pacto por la igualdad a las mujeres y sus derechos en el centro no puede ser de otro modo nos abstendremos en el resto de las propuestas ya que a pesar de no tener la profundidad u orientación que nos gustaría en esta materia consideramos prioritario mantener vías de diálogo abiertas y en este sentido no quiero acabar sin recordar al señor urrutia

tomo la suya también espero que este compromiso de dialogar sobre conceptos y temas se ponga sobre la mesa y se concrete en algo claro y efectivo

de este parlamento y se vea reflejado también en la votación a las propuestas de hoy por último no menos importante agradecer sinceramente la voluntad de todos los grupos y también del gobierno de llegar a los acuerdos que hoy han facilitado que logremos aprobar las propuestas de resolución

bueno hoy creo

nos tendríamos que felicitar por haber conseguido un amplio consenso en muchas de las resoluciones donde se abordan las principales políticas públicas en las que vamos a tener que pivotar en el futuro

infancia y desarrollo demográfico en estas resoluciones se parte además al igual que en el pacto de familia recientemente firmado del reconocimiento profundo

inmersas las estructuras familiares las trayectorias de vida familiar

que todas las estructuras familiares cuenten con el mismo grado

de esta forma damos un paso importante para el consenso institucional

que se llevó a cabo en la firma del pacto recientemente en enero vamos a conseguir hoy aquí un consenso mayoritario en el ámbito político en muchas de las resoluciones

y que se recogía esta adhesión dentro

presentada por el grupo nacionalista vasco y el grupo

mucho más allá es importante porque se suma ya al pacto que ya se había llegado

porque todas ellas deben de contar también con un consenso político que permita mantener

los problemas existentes en el presente y garantizar una igualdad real y efectiva de todos los miembros de la familia en el futuro que ahora no se dan

porque hemos conseguido con el esfuerzo de todos un amplio consenso en muchas de estas

que se van a aprobar hoy aquí y en la que hemos trabajado y hemos dedicado mucho tiempo los diferentes grupos de esta cámara las resoluciones donde no se ha encontrado un acuerdo han sido debidas en muchos casos por tratarse de políticas o acciones que se vienen

y no podían aparecer como que se tenían que iniciar a partir de ahora

consideramos que no era necesario incluirlas porque

algunas de ellas recientemente dentro de modificaciones normativas en trámite como en el caso del proyecto de reforma de la renta de garantía de ingresos e inclusión que abordaremos y debatiremos próximamente también en este parlamento

sin mezclar en algunos casos otras cuestiones

nacionalista vasco y el grupo socialista nuestras propuestas se recogen

resoluciones son propuestas muy amplias y muy transversales que abarcan a diferentes departamentos

gobierno vasco para seguir avanzando en la igualdad no solo de la mujer sino de oportunidades también en el ámbito socio económico

y en este sentido consideramos que la propuesta para extender el permiso de parentalidad intransferible y las iniciativas sobre el teletrabajo

pública deben trasladarse al conjunto de la actividad económica y productiva incluyendo si fuera necesario los cambios legales que fueran pertinentes

socialista hemos dado mucha importancia a la inclusión de una en la que se recogía la necesidad de instar al gobierno vasco la creación de un grupo de trabajo interinstitucional en el marco del consejo vasco de finanzas

integrada las prestaciones de hijo o hija y las deducciones fiscales

con especial atención a los efectos de las rentas más bajas algo a lo que mi grupo

se incluye un amplio número de medidas también para los jóvenes incluye también que ese inste

emancipación juvenil para facilitar la formación de unidades familiares y que los jóvenes puedan

sin tener que posponer la decisión de tener sus hijos por motivos económicos o de vivienda por ello se incluyen resoluciones donde se insta al gobierno en aras a impulsar a la emancipación juvenil de la juventud vasca y a facilitar a este colectivo el acceso vivienda preferentemente en alquiler y a establecer una reserva preferente de vivienda protegida para el colectivo joven por ello

este colectivo como colectivo prioritario en el desarrollo del decreto normativo que regula el derecho subjetivo a la vivienda y se revisará la orden de quince de octubre de dos mil doce del consejero de vivienda obras públicas y transporte

donde se regula el régimen de baremación de la adjudicación de vivienda protegida

también se instaba al gobierno vasco a desarrollar nuevas fórmulas y medidas orientadas a favorecer el alquiler juvenil y ofrecer a personas jóvenes diferentes alternativas que den respuestas a sus necesidades de sus diferentes etapas vitales fórmulas y medidas tales como favorecer el desarrollo de alojamientos dotacionales

los que se agrupen y se presenten al programa impulsar iniciativas de convivencia intergeneracional y definir un programa de masovería urbana plantea en las resolución que

sociales educativos sanitarios y de cuidado infantil de mediación en conflictos con el fin de facilitar las resoluciones de conflictos que puedan dar en el seno de las familias

en condiciones de igualdad a una oferta más amplia de recurso y equipamientos socioeducativos deportivos culturales y de ocio

corresponsable marcando las directrices generales por donde hay que avanzar también se insta al gobierno vasco a mejorar las

e infancia y estableciendo indicadores de evaluaciones anuales con el fin de poder examinar los avances que vayan dando incluyendo del cuarto plan de apoyo a las familias

a la colaboración estrecha y permanente entre con el resto de instituciones con el fin de dar una más amplia respuesta a las necesidades de las familias vascas y también en el ámbito de la negociación colectiva se le insta al gobierno vasco

sindicales de la comunidad autónoma vasca con el fin de que se incluyan medidas de conciliación de la vida laboral y familiar dentro

a impulsar un sistema de premios y reconocimientos de las empresas que impulsen planes de flexibilización de los horarios de trabajo y

educativo también se le insta al gobierno a seguir profundizando en políticas educativas con el fin de avanzar en un sistema escolar inclusivo

y en este sentido se insta al departamento de educación

punto al que mi grupo le ha dado especial importancia por otra parte es importante señalar que

esto ya lo he comentado

respecto de las propuestas del grupo eh bildu he de señalar que me sorprende que por parte del grupo proponente

como he señalado de tratamiento y que se van a abordar dentro de reformas que están ya iniciadas como he dicho anteriormente como por ejemplo la reforma de la rgi

se pedían cambiar normas como el decreto de atención temprana que está recientemente aprobado y que lo que hay que hacer a nuestro juicio es

otra vez otro nuevo o sobre la realización de un plan de choque juvenil porque contamos con uno recientemente y no tiene ningún sentido la realización de otro nuevo o en el ámbito del estudio o cambios

conseguido un acuerdo mayoritario sin embargo en una serie de batería de resoluciones importantes como incorporar en diputaciones

todos los servicios y prestaciones dirigidas a las familias la apuesta por un ejemplo de calidad para poder avanzar en la conciliación

adquisitivo o la elaboración de un plan de relevo

empleo de calidad en general y los sectores más feminizados en particular

incluidas en las resoluciones propuestas por el partido nacionalista vasco y el partido socialista como puede ser en la referencia

juvenil y referencias también a las haurreskolas o medidas de protección a las familias más

matrimoniales o parejas del mismo sexo y luego también hemos acordado

hemos llegado a un acuerdo campañas de sensibilización sobre violencia contra

con respecto al partido popular pues también hemos

llegar a acuerdo en una serie de resoluciones como pueden ser también el establecer el sistema de indicadores

como no podía ser menos porque nosotros también incluíamos además una de nuestras propuestas que hacía referencia expresamente también a la importancia y a la necesidad de estos indicadores

de los recursos que se ofrezcan a las mismas impulsar y dotar de contenido

o referentes al impulso y fomento de acceso a las familias

o a desarrollar un programa de información difusión de los beneficios de la responsabilidad social empresarial y responsabilidad social corporativa o también de realización de campañas de sensibilización en conciliación con responsabilidad y parentalidad positiva y también por ejemplo en

necesidad de realizar un plan de prevención de la obesidad infantil entre otros no hemos llegado a acuerdos

de este monográfico por no tener que ver con políticas familiares o porque se recogían en otras propuestas que considerábamos que estaban recogidas de una forma

mejor como puede ser en la referencia a las deducciones fiscales a nosotros nos parecía que estaba era mucho mejor la propuesta que se presentaba y que se presenta por el partido nacionalista vasco y el partido socialista

competentes un sistema de prestaciones económicas para las familias con hijos e hijas que integre las deducciones por descendientes del impuesto de la renta de las personas físicas y las ayudas directas que concede el gobierno vasco para mejorar prestaciones y avanzar en el cumplimiento

de apoyo a las familias del dos mil ocho además de la referencia que he hecho yo anteriormente

de la creación de ese grupo de trabajo institucional dentro del consejo vasco de finanzas respecto a las propuestas de

tengo que señalar que hemos conseguido también acordar muchas resoluciones algunas que ahondan en el reconocimiento de principios generales de igualdad de trato

ahondar en la promoción de la corresponsabilidad

de la juventud que para nosotros son también fundamentales y también en el ámbito del desarrollo de políticas en el ámbito rural

de violencia en diferentes ámbitos y medidas para reconocer y apoyar la diversidad familiar alguna que se ha aceptado como la referente para desarrollar y favorecer

procesos de revictimismo aunque hay que decir que en estos momentos ya se viene haciendo para nosotros nos parecía importante seguir ahondando en ello y por tanto aunque ya se estaba

que se recogiera la referencia al mismo hemos rechazado otras por considerar que no tienen encuadre dentro de este

también resoluciones que tienen un encaje no aquí sino dentro también como he dicho en la referencia a las resoluciones de otros grupos

que desarrolla la ley de vivienda por nuestra parte agradecer todo el esfuerzo yo creo que todos los grupos hemos realizado por llegar a un amplio consenso para conseguir que el resultado de todas las resoluciones que se van a aprobar

dentro de este pleno monográfico pues favorezcan seguir avanzando en políticas de igualdad en el futuro que

urrutia yo creo que ha faltado ambición en este pleno yo creo que teníamos hoy una oportunidad de poner en el centro de la política vasca

y yo desde luego no me quedo satisfecha creo que desde el grupo popular hemos hecho un planteamiento muy ambicioso y lamento que desde luego

no va a ser absolutamente satisfactorio porque no hace hincapié realmente en los problemas que tenemos como sociedad

desde luego no de españa de europa sino del mundo la más baja

vivimos más que eso está muy bien una tasa de envejecimiento de la población también muy alta

de cuidados y un gasto sanitario y social que debe acompañar a la necesidad

está muy bien que se vayan a ver mundo a formarse fuera pero los jóvenes no vuelven al país vasco es decir estamos dejando de ser atractivos para los jóvenes que buscan otros lugares para hacer sus proyectos de vida y no retornan al país vasco por lo tanto no tenemos un panorama muy optimista y creo que hoy pues

pero creo que hoy era un pleno para haber sido muchísimo más ambiciosos y así modestamente lo pretendían las propuestas del partido popular

posibilidad de aproximación no ha habido posibilidad de acordar o llegar a un acuerdo en relación a la propuesta del partido popular del cheque fiscal vinculado a la declaración de la renta independientemente de su resultado

deducciones actualmente existentes por hijo en la declaración de la renta que desde luego era una propuesta mucho más ambiciosa que la que presentaba eh bildu que se quedaba en los mil quinientos

añadidos a las deducciones actualmente existentes creo que es

tomaron medidas en este sentido creo que nosotros y los análisis que se han hecho por parte de los gobiernos de la comunidad autónoma del país vasco y los objetivos plasmados en los diferentes planes de familia y especialmente en el último iban orientados en esa dirección pero

falta de voluntad política en relación a atajar y poner soluciones efectivas a los problemas

vascas por eso no podemos tener no podemos estar satisfechos con este pleno vamos a aprobar indudablemente pues bastantes propuestas de resolución pero

hemos perdido una oportunidad de incidir realmente en los problemas que tenemos como sociedad como sociedad vasca otra propuesta

una enmienda de transacción de bildu y podemos también se nos queda corta porque habla de que al acceso al consorcio haurreskolak como un primer paso hacia la gratuidad y

creo que la propuesta del partido popular era muchísimo más ambiciosa

del primer ciclo de educación infantil concertado en el tramo de dos a tres años

educativo por lo tanto no nos vamos a oponer obviamente pero creo que en relación a la propuesta del partido popular que ustedes tenían encima de la mesa y que me imagino que habrán

leído detenidamente creo que la nuestra es mucho más ambiciosa

sino que hace frente a los retos que tenemos como sociedad voy acabando señora

me hacía referencia la señora sánchez también al tema de las deducciones que llevan una especie de estudio propuesta creo señora

señora guanche hacía referencia a que no le gusta el pacto por la conciliación de igualdad del partido popular creo que la igualdad es una

y yo creo que la propuesta del partido popular bueno pues hacía referencia a esa cuestión y a una necesidad de un gran pacto en toda la sociedad

pero sí que lamentamos que este pleno a nuestro entender no haya servido para hacer

una sociedad envejecida los problemas de natalidad que tenemos y desde luego no convergemos con europa un gobierno que tanto le gusta mirar a europa eskerrik asko garrido andrea

garrido antes nos ha hecho al inicio de su exposición una

quiero hacerle una también a usted sobre el concepto de universalidad que ya le decía esta mañana que creo que el suyo parcela bastante y también sobre cuando habla de políticas de retorno

las miles y miles de personas que se han tenido que marchar tanto de euskadi como del estado español dicho esto lo que yo he mencionado sobre el pacto de igualdad era que usted no puede poner en el centro de un pacto de igualdad las políticas demográficas porque en un pacto de igualdad lo que tiene que estar en el centro son los derechos de las mujeres

y para terminar y simplemente porque me voy con un cierto grado de preocupación

de todo todas hemos acordado que hablamos de multidimensionalidad y todas hemos acordado

mirar a largo dialogar dejemos de parcelar por tanto lo que cabe o no cabe

insistimos tienen que ver con el bienestar de las personas besterik ez mila esker eskerrik asko

sánchez andrea bai bertatik sí también desde el escaño yo creo que

muy clara todas las posturas yo creo que con las resoluciones que se van a aprobar hoy sí que se ha pasado a la acción son resoluciones bastante amplias que

a muchos departamentos y a muchos ámbitos de las diferentes políticas

que hay que abordar para corregir a futuro la situación actual

yo sin más agradecer todo el esfuerzo que hemos realizado todos que yo creo que ha sido importante y bueno pues las resoluciones que se van a aprobar son muy amplias y tocan

positivas para ser tenidas en cuentas luego en el cuarto plan para las familias nada más

ambición falta de ambición creo que he respondido a esto antes a la mañana la falta de ambición yo considero que estaba en